de los candidatos y candidatas que se han presentado para los diferentes órganos de la mesa presidencia

la presenta el partido nacionalista vasco y también

vox para las vicepresidencias primera y segunda

hay cuatro candidatos iñigo iturrate lo presenta el partido nacionalista vasco gustavo angulo

laura garrido de la coalición partido popular ciudadanos

vox en todo caso en cada una de las elecciones iré dando los nombres de las personas que hay que votar vamos a comenzar por la elección de presidenta

que cada parlamentario o parlamentaria debe escribir un solo nombre en la papeleta que se va a repartir

de los miembros de la cámara el vicepresidente primero sacará una bola con el orden del comienzo de la votación

cincuenta y cinco de nuevo mikel otero gabirondo que ya comenzó hace cuatro años con la votación

la secretaria primera iniciará por su nombre y se acercan a la urna y

irurogeitia amabost votos a favor de bakartxo tejeria otermin

un voto bat boto suria votos en blanco

ogeita amallur amairu votos en blanco

en consecuencia habiendo obtenido la mayoría absoluta de los miembros de la cámara la señora bakartxo tejeria otermin ha resultado elegida presidenta del parlamento vasco

vamos a proceder a la elección de los dos vicepresidentes o vicepresidentas de forma simultánea

que cada parlamentario o parlamentaria debe escribir un solo nombre en la papeleta que se va a repartir o ya la tienen repartida en este caso resultarán elegidos o elegidas por orden correlativo los dos parlamentarios o parlamentarias que el mayor número de votos como les he trasladado

rato hay tres candidatos

eva blanco de angulo y amaia martínez grisaleña la votación empezará con la bola que saque nuestro vicepresidente número hamazazpi jone berriozabal secretaria primera

irurogeita ama bost votos a favor de charli prieto san vicente cuarenta y uno votos

votos a favor de eva blanco de angulo veintiuno votos hogeitabat boto

amabi boto en consecuencia ha resultado elegido como vicepresidente primero don txarli prieto san vicente

eba blanco de angulo pasamos por tanto a la siguiente votación de los miembros de las secretarías primera y segunda voy a recordar de nuevo los candidatos y candidatas

y amaia martínez vamos a proceder por tanto como es en los demás casos a la votación pero antes

los dos parlamentarios o dos parlamentarias que obtengan el mayor número de votos el vicepresidente sacará la bola que comenzará por el número treinta y siete maialen gurrutxaga uranga

ogeita amasaspi votos a favor de gustavo angulo garcía once

amaika boto votos a favor de laura garrido

knorr seis votos sei boto votos a favor de amaia martinez bat boto votos en blanco veinte hogei boto en consecuencia ha resultado

primero don iñigo iturrate ibarra y como secretario segundo

angulo garcía por tanto realizadas todas las votaciones

queda proclamada de la siguiente manera lehendakaria

guztioi con ello cesan las funciones de la mesa de edad e invito a las personas proclamadas a ocupar sus puestos en la mesa

esa es nuestra prioridad en estos momentos adoptar las medidas necesarias para reactivar la economía empleo atender a las personas más vulnerables tenemos que garantizar que todas y todos los que viven en este país salgan adelante en la medida

que todo el mundo pueda superar esta crisis en unas condiciones dignas

lo tenemos que hacer entre todas y todos la colaboración resulta

esta legislatura va a exigir acuerdos amplios más que nunca acuerdos interinstitucionales y acuerdos entre todos los agentes políticos y sociales y confío

colaboraremos con el objetivo común de que este país salga adelante y salga fortalecido ez gara hutsetik abiatzen herri sendoa gara

unea iritsi da cuatro décadas después de la aprobación del estatuto de gernika

necesitamos actualizar nuestro autogobierno necesitamos actualizarlo para garantizar los derechos políticos económicos sociales lingüísticos y culturales de la ciudadanía vasca

resulta imprescindible un nuevo modelo de relación con el estado

la bilateralidad y el pacto necesitamos que se respete lo que las vascas y los vascos decidamos durante las dos últimas legislaturas el parlamento ha estado trabajando en esa actualización ahora